agencia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción de la comunidad valenciana oficina independiente de la regulación y supervisión de la contratación

corrado alvaro sostenía que la peor desesperación de una sociedad es la duda de si vivir honestamente resulta inútil eta uste dugu horregatik ere

zeren ondorioak ikusi besterik ez daude ya sabes tienes que pasar por caja kasuan

la misma que la legislatura pasada la misma que tuvimos tras el recurso orquestado por las diputaciones ante la comisión arbitral

secuestrada la modificamos y con informe favorable del letrado de la cámara siguió

exactamente casi exactamente la misma porque la única modificación que presenta es en lo referente a la protección de las personas denunciantes en consonancia

del parlamento europeo y del consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la unión y esta última cuestión es decir el cumplimiento de una directiva europea no puede ser motivo para el cambio de criterio que este gobierno ha tenido y me explico

ya que con la finalización de la anterior legislatura decayó lo lógico sería pensar

a menos que les convenzamos en este turno de favor en la anterior ocasión la propuesta recibió criterio favorable

y la pregunta es qué ha cambiado qué ha cambiado desde entonces la mayoría absoluta

que estábamos en aquel entonces en medio del caso de miguel

por el juzgado o que este gobierno tuvo que emitir criterio a los pocos días de la condena al exalcalde y cargos del pnv

eso ha cambiado porque esto no puede depender ni del contexto ni de intereses partidistas o estás en contra de la corrupción

de los cárteles del clientelismo de las corruptelas y de los tratos de favor o en cierta medida eres connivente permitiéndola y no adoptando medidas para su erradicación

se enumeran los mismos elementos a tener en cuenta pero hace dos años favorable

desfavorable con los mismos elementos se cita la ley de transparencia esa que por tercera legislatura consecutiva parece que va a tramitarse en la cámara en aquel entonces se estaba tramitando hoy por hoy

veremos una ley que sobre todo incide en hacer más accesible la información y contenidos en pro de la transparencia vale y está muy bien está muy bien

se citan los órganos de control y fiscalización la oficina de control económico y el tribunal vasco de cuentas públicas órganos que se limitan a los contratos

otra pequeña parte y que están inhabilitados actualmente por su absoluta falta de independencia como antes he comentado

como organismos de lucha contra la corrupción o prácticas irregulares su aportación es limitada y también se mete el ararteko y el defensor del pueblo del estado por medio

en relación ante las quejas sobre las actuaciones de la administración cuántos casos de prácticas irregulares o de corrupción en todos estos años

por cierto un ararteko que no recibe

ni respuesta en el cincuenta y tres por ciento de

los escritos que remite a la administración pública vasca al gobierno vasco

ni respuesta no es ya que se haga caso a lo que determina a sus conclusiones

de los escritos que remite a este gobierno entonces

elemento también de existencia para excusarse en la no necesidad de esta oficina

parece un poco cuanto menos no irrisorio sino de falta de respeto hacia el propio ararteko

de los entes y órganos que se enumeran en esta comisión está la comisión ética o de estética

a estas alturas paso de perder el tiempo hablando de la misma y se habla de duplicidad de órganos

y no se puede duplicar lo que no existe no hay duplicidad no se puede duplicar lo que no existe los órganos que cita al gobierno vasco no tienen ni funciones ni competencias que le dota a esta oficina la ley y habla finalmente este dictamen para terminar

escasa eficacia y no sabemos realmente no sabemos y esto nos preocupa en qué se basa para emitir tal afirmación

en la tramitación de la modificación de la ley del tribunal vasco de cuentas públicas que estamos llevando a cabo han pasado por aquí

los presidentes de las oficinas anticorrupción en europa también y la conclusión es la contraria

un cambio de criterio de un día para otro que difícilmente se puede comprender aurreko

en la anterior tramitación de esta ley dijo que el grupo socialista es favorable a que este parlamento valore la creación de una oficina de buenas prácticas y anticorrupción y lo es

en consonancia con lo que está promoviendo el partido socialista en el resto de españa y de hecho esta propuesta recoge literalmente propuestas ya llevadas a cabo en otras comunidades

iniciativas que impulsamos desde el gobierno de euskadi cuando estuvieron continúa qué ha cambiado señor pastor

qué es lo que ha cambiado qué novedades ha habido entre la emisión del criterio favorable

y la emisión del criterio desfavorable firmado por la consejera garamendi el quince de octubre de dos mil veinte en estos dos años sabéis qué ha cambiado

se dictó la sentencia del caso de miguel el mayor caso de corrupción que afecta a la cúpula del partido nacionalista vasco en araba eso ha habido en estos dos años

también ha habido otra sentencia con el caso balenciaga

eso ha habido entre estos dos años de cambio de criterio y claro

solicitando a las administraciones e instituciones públicas vascas información porque se estaba investigando un posible cártel como finalmente

que ha sido así este tipo de cuestiones es decir la cosa no ha ido a menos la cosa ha ido a más

erregenerazio demokratikoan sinesten dugulako eta horren alde egiten dugulako zalantzarik gabe entendiendo además la regeneración democrática en congruencia con la idea de xavier

es un combate ético político y sociocultural baina ez dugu jarrera

un gobierno instalado acomodado en gestionar lo viejo y que desecha lo nuevo eta

que se opone al cambio aferrada a unos valores que miran con recelo las alteraciones de un orden establecido pero pronto

los cimientos de esta imposición no impongan su mayoría absoluta no bloqueen la tramitación de esta ley que beneficia al conjunto de la sociedad vasca la semana pasada ustedes

conocidas como el cártel del norte para que determinase entre otras cosas
si ha existido connivencia o no por parte amaitu mesedez de algunas administraciones le dieron portazo

gogorrenean eta garbienean aritzea la corrupción es un fenómeno complejo que adopta muchas caras es escurridiza y se renueva constantemente buscando

siempre de los controles y de las medidas que se establecen en su contra y intenta siempre también explorar nuevas posibilidades que encuentra a su paso

y por eso en cada lugar se debe abordar de una manera

y euskadi no es un oasis sin embargo puede decirse que lamentablemente en euskadi no se ha avanzado

impedir que estas formas nuevas de corrupción esta adaptación de las formas de corrupción se paren

sortzearen honen inguruan gobernuak kontrako irizpidea eman duela rechazada la fiscalía anticorrupción rechazada la protección a los que denuncian corrupción rechazada

la oficina anticorrupción y lo que a mí me parece teniendo en cuenta nuestro deber por explorar todas las vías posibles

esa corrupción que sí que explora todas las vías posibles para eludir todo tipo de control por qué no se ve necesaria esta oficina por qué no se ven necesarios

podría decirse que en principio todo lo que sea contar con más recursos para investigar y para mejorar la calidad de nuestra democracia está bien lo que habría que explicar ciertamente y mucho es lo contrario por qué no defender

de organismos el poner obstáculos a que estos organismos existan pues se entiende mal y hace pensar mal

que la corrupción tiene múltiples caras y sabemos efectivamente que no toda la corrupción tiene que ver con sobres de dinero

por ejemplo que han ocurrido fenómenos como el del cártel de los comedores en el que había un puñado de empresas que se repartían los servicios del jantoki escolar como bandas organizadas y eso también es corrupción también hace poco en la legislatura pasada aquí conocemos el escándalo de las ope

había unos pocos elegidos que tenían las preguntas de las oposiciones de antemano y esto también es corrupción también tenemos corrupción clásica

hiriko es decir en euskadi también tenemos corrupción y recientemente muy recientemente todavía estamos conociendo hemos conocido y estamos conociendo que

se ha sancionado a un cártel de consultoras más de una veintena de empresas que se han repartido como mínimo doscientos millónes de euros en contratos públicos

administrativas tenían información privilegiada

los mecanismos de control los dispositivos jurídicos e institucionales que se supone que tenemos para controlar todas estas actividades

de estos organismos con los que contamos hoy era el que tenía que haber previsto las prácticas de este cártel de consultoras y que no lo ha hecho quién está investigando

y otra cosa quién está diseñando medidas que hacen falta para que esto no vuelva a suceder gobernuak

que tenemos en estos momentos para controlar la corrupción un control a posteriori también es por ejemplo el que brinda el tribunal vasco de cuentas públicas que analiza las cuentas anuales de nuestras instituciones después de que estas cuentas están ya cerradas

sabemos que en este parlamento se está tramitando se ha hecho referencia también la modificación de este tribunal y en este proceso hemos podido escuchar voces expertas

organismos equivalentes al que hoy se pretendería crear con esta ley y todos todas a favor de este tipo de oficinas y de su complementariedad además con otros órganos de control en euskadi no tenemos

tenemos órganos de control a posteriori que no terminan de funcionar del todo bien y desde luego no tenemos órganos de prevención y esta oficina

de los que ya disponemos lo decía antes la corrupción se mueve

nuevas formas hay nuevas formas de corrupción que sortean

establecidos los mecanismos existentes y se necesitan constantemente para poder combatirla con eficacia creo que hoy tenemos una oportunidad para abrir el camino y dotarnos de una herramienta que sí que necesitamos que sea acorde a los nuevos tiempos y que se ha probado que es además útil y necesaria también

es por todo esto que nuestro grupo hoy votará a favor de esta proposición de ley eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi andrea

el historial que se ha ido relatando del nacionalismo vasco pero carece de sentido hacerlo con una oficina dirigida por ellos con personal elegido a dedo

de hacerse realidad esta oficina asistiríamos al nacimiento de un nuevo chiringuito más gasto para una ciudadanía ya ahogada por el sobrecoste de entidades y oficinas innecesarias solo para satisfacción del nacionalismo vasco en el poder imaginémonos por ejemplo una oficina nacionalista o abertzale

así que hemos votado en contra de la toma en consideración de este proyecto de ley pero dejando meridianamente claro que entendemos que hay que luchar contra la corrupción en serio modificando los protocolos anticorrupción por ineficaces
y dotándonos de herramientas eficaces para acabar con esta lacra que todos los vascos asumimos gracias eskerrik asko

muchas gracias señora presidenta nuestro grupo se ha abstenido al igual que hizo cuando se presentó inicialmente esta propuesta

se ha abstenido de la misma forma porque en esencia los argumentos

siguen siendo válidos a pesar de que la situación en lo que atañe a los casos de corrupción que estamos conociendo

empeorando se están haciendo más públicos y más graves extraña el cambio de parecer del criterio del gobierno

y extraña también el cambio de parecer de algunos grupos que en su momento

y ahora parece que cambian o alteran el sentido del voto

la lucha contra la corrupción necesita de tres elementos tres elementos fundamentales en primer lugar

social y política no solamente de las conductas corruptas que evidentemente son constitutivas de delito sino de las conductas seudocorruptas irregulares

deslegitimación social y política en primer lugar en segundo lugar es necesario reforzar

la profesionalidad de los órganos de control y aquí es fundamental el establecer sistemas y el ver cómo se eligen o cómo se designa

órganos de control el tercer punto consiste en reforzar la vía judicial dar más medios a los jueces dar más medios a la fiscalía

contra la corrupción o una fiscalía anticorrupción mejor dicho mejorar

y demás nosotros optamos por estas tres vías evidentemente sin necesidad de crear nuevos órganos manteniendo estos tres principios y desarrollándolos

nosotros compartimos el diagnóstico de la necesidad de luchar contra la corrupción y de la necesidad sobre todo deslegitimar

estos casos de corrupción de corruptelas que se están dando son situaciones son conductas muy graves porque creemos que la creación de un organismo como el que se ha propuesto en la oficina de buenas prácticas y lucha contra la corrupción en realidad no serviría para nada si no se cumplen otras de las características pues miren es muy fácil

que pueden tener una finalidad positiva a largo plazo pero que va a depender muchísimo es casi una lotería va a depender muchísimo de la persona que los acabe dirigiendo lo hemos visto en casos muy recientes

una serie de controles preventivos establecer un órgano con un nombre que pueda ser más o menos adecuado

contra las prácticas corruptas pero claro si luego por mayoría absoluta se elige a su director y quien tiene mayoría absoluta es el gobierno

por eso hay tres elementos en primer lugar la deslegitimación social y política de este tipo de conductas lo hemos visto recientemente si ante una situación grave en la que se ha visto claramente que ha habido situaciones de irregularidad prácticas que por una razón u otra no hayan podido ser sancionadas penalmente eso no obsta

el gobierno tuvo una oportunidad clara aquí con el caso que se ha mencionado antes del carácter de las consultoras destapado por la cnmc de hacerlo de crear una comisión

adoptó el papel de ser el abogado de las partes independencia y profesionalidad

de este tipo si primero no perfilamos muy bien cómo tienen que ser este tipo de órganos a través por ejemplo de la ley que se está discutiendo ahora que es la ley del sector público vasco nosotros ahí

hay que reforzar la vía judicial la vía judicial la fiscalía y los medios de que dispone la policía la fiscalía anticorrupción que se ha propuesto y tantas veces se ha rechazado pero una fiscalía anticorrupción específica que estén los tribunales superiores de justicia y sobre todo bien dotada

nuestro grupo presentó una serie de enmiendas para mejorar su formación etcétera

de la existencia de una oficina de estas características pero creemos que con los recursos que tenemos hay que poner énfasis en otros

es el de reforzar la vía judicial la vía de la fiscalía y la vía de la policía muchas gracias eskerrik asko gordillo jauna

gracias señora presidenta bueno hoy el señor estarrona ha tenido que dar una voltereta en el vacío para explicar por qué descongela una iniciativa que lleva en el congelador más de nueve meses

ha comentado que estaba en un plan no sé si ahora tiene un calendario legislativo eh bildu perfecto pero a ojos de cualquier espectador a nadie se le oculta que esto forma parte de una

en el pleno pasado cuando se acabó en el punto relativo a las sanciones de la comisión nacional del mercado de la competencia dijo que hacía falta un nuevo órgano usted concluyó así está bailando esa estrategia perfecta que ustedes

el pasado jueves porque además aquí no toca ningún debate toca explicar simplemente la posición del voto y además porque lo hizo perfectamente mi compañera

que pretende plantear eh bildu sobre todos los órganos de control previo

qué son los interventores y los secretarios municipales qué son los órganos y las mesas de contratación

contra los órganos de control a posterior el tribunal vasco

la comisión de la competencia la autoridad vasca de la competencia y los propios jueces o fiscales y nosotros tampoco podemos compartir la sombra de sospecha

lanzar continuamente sobre todo este tipo de órganos lo dijimos muy claramente el jueves pasado es innegable que en ocasiones

e incluso ilícitos pero de ahí a plantear

o que la actuación general de esos órganos de control previo y de control posterior es la de mirar para otro lado

delitos los cientos y miles de funcionarios técnicos y gestores públicos que ahí están y nosotros no podemos compartir ni mucho menos eso que es lo que se plantea parece que eh bildu entiende que todo esto se solucionaría con la creación de una y yo le tengo que decir que ha hecho algo bastante feo usted ha hablado de un debate anterior pero sin leer

con respecto a esto le voy a leer la página doce del diario de sesiones ciento nueve de fecha de dos mil dieciocho lo que le dijo el señor pastor somos por tanto favorables a la tramitación de esta ley por sus intenciones aunque en su definición nos parece que se aleja del proyecto más ambicioso que creo que ya estamos trabajando en la ley de transparencia

una ley por cierto quiero recordar que tiene descartada tal y como propusimos nosotros la creación de una agencia específica que como es conocido en otras comunidades no ha sido el instrumento más eficaz en lograr lo que aquí se nos propone y no es una posición que tengamos ahora cuando en la anterior legislatura se nos planteó la creación de una agencia específica para la vigilancia de actividades administrativas

que era más interesante que esas funciones se incorporasen a la agencia de protección de datos el debate que nos propone eh bildu y al que accedemos pasa por que hagamos una reflexión de si necesitamos un órgano fiscalizador para cada cosa o si es preferible

entre entidades ya existentes con la misma labor como el tribunal de cuentas el ararteko las diferentes comisiones de ética pública existentes en distintas instituciones fiscalía que es lo que defendemos decía usted que el debate es de un combate ético pues para eso deberían comenzar por decir la verdad nosotros entendemos que hay muchas cosas que hacer y que tenemos que seguir haciendo

ir por el ámbito de la contratación y por el ámbito de reforzar la transparencia la supresión de los contratos negociados sin publicidad por razón de cuantía

pero con ello creemos necesario desde euskadi seguir abordando medidas concretas de compromiso con los valores de la transparencia y el buen gobierno en este sentido tal y como ya conocen dentro del calendario legislativo remitido por este parlamento y tal como se recoge en el acuerdo de gobierno

con la misma postura que los socialistas mantuvimos en el año dos mil dieciocho

usted se lo ha inventado eskerrik asko rico jauna

un modelo más represivo que preventivo y nosotros y nosotras entendemos que la dimensión preventiva ha de ser la predominante ya que es el aspecto más importante a desarrollar y es precisamente

lleva años implementando es por ustedes bien conocido que el modelo por el que apostamos

institucional y no solo pensando en los cargos públicos sino también para el empleo público y para aquellos agentes que operan con la administración ibilbide erraza

ibilbide zaila deitzen duena ibilbide zaila esta proposición de ley supone además apostar por modelos

pero lo que no es menos cierto es que lamentablemente no se está revelando todo lo eficiente que se esperaba no siempre por causas endógenas

que limitan en estos momentos y a día de hoy su efectividad y el objetivo para el que fueron creadas hay oficinas en nafarroa en cataluña

funciones y en el caso de galicia es su tribunal de cuentas quien tiene asignadas algunas de las funciones comunes a otras oficinas aurreko

tenemos instrumentos internos de fiscalización y control económico presupuestario en el caso de la administración general la oficina de control económico

etcétera tribunal vasco de cuentas no voy a seguir con la lista ustedes la conocen tenemos también el servicio de registro de personal el código ético y de conducta de los cargos públicos la comisión de ética pública la comisión vasca de acceso a la información y además

como ven un panorama cuando menos denso denso no creemos que resulte pertinente crear

que supongan una superposición de modelos porque este hecho seguramente implicaría una menor efectividad y que a día de hoy

cuestiones debido como he dicho anteriormente a limitaciones legales no pueden intervenir en la manera para la que fueron o con la que fueron concebidas gure botoa kontuan hartzearen aurkakoa izan da

gracias señora presidenta buenos días a todos señoras y señores parlamentarios la economía vasca según el eustat ha perdido más de siete mil millónes de euros lo dice el eustat

millónes de euros es decir más

el país vasco jamás ha sufrido un retroceso igual en su economía y de nuevo en el parlamento vasco nos vemos obligados

el gobierno vasco derrocha el dinero público en la creación de chiringuitos con la que está cayendo señorías con la que está cayendo

el partido nacionalista vasco en la creación de entramados opacos chiringuitos que les permite colocar a los suyos aquí y haya no es corrupción ilegal claro que no

la ley ampara esta forma torticera de derrochar dinero pero es indudablemente inmoral es inmoral

para crear este chiringuito dinero de todos los vascos derrochado cuando además más del ochenta y cinco por ciento de la población

a los del partido sí al resto crisis miseria y ruina un ejemplo les daré

vox otorgaría ayudas de seiscientos euros a todos los hosteleros alaveses cifra por supuesto insuficiente pero mejor en el bolsillo

del problema insolidaridad duplicidades ineficiencia desigualdad y despilfarro

autónomas diecisiete sistemas en competencia con diecisiete clases políticas que compiten por ver dónde colocar a los amigos de turno los españoles podríamos ahorrar cada año más

que se gastan las autonomías sin que los ciudadanos pierdan ningún servicio repito ningún servicio entre todos tenemos que mantener diecisiete sistemas diecisiete legislaciones y eso cuesta dinero dinero que va del bolsillo de los ciudadanos al de los políticos
nuestro país señorías tiene una grave enfermedad y se llama estado de las autonomías eskerrik asko

miren la fundación opengela no puede ser un vehículo para sustituir la acción pública responsabilidad del gobierno vasco

privada financiada por fondos públicos son los propios estatutos de la fundación los que dicen en el artículo tres fines fundacionales

actuar como órgano gestor de recursos públicos y privados que pudieran destinarse a estos fines que son y vuelvo a citar textualmente contribuir en el diseño

de regeneración renovación y rehabilitación del patrimonio

es decir la fundación opengela no aporta nada nuevo a la sociedad solo sustituye a la misma porque es

que lo tiene que subcontratar a una fundación y desconocemos los recursos con los que va a contar la fundación opengela es decir los recursos humanos y las personas que van a trabajar en ella

antes de definir los medios que va a disponer la fundación ya se ha asegurado dos puestos en el patronato ya está hasta aquí el trabajo del gobierno vasco

y en dos mil veintidós y dos mil veintitrés nos va a costar un millón cada año

y aquí las preguntas que me surgen son cómo va a cumplir la fundación opengela con los fines definidos en los estatutos por qué tiene que hacerlo opengela

igual el problema está en asumir que el departamento esa administración competente

si tiene que subcontratar su trabajo es una administración incompetente el gobierno vasco no tiene que tener mucha confianza en el proyecto cuando

en el mismo antes de empezar según el informe de ejecución presupuestaria de mayo la partida para opengela en dos mil veintiuno ha pasado de ochocientos cincuenta mil a zazpiehun eta berrogeita hamar mila y la verdad que nos alegramos porque

que dejamos de gastar en funciones propias del departamento pero dice mucho de la improvisación

antes de empezar ya han recortado la financiación un once coma siete por ciento pues a ver si tenemos suerte y con un par de recortes más dejan ustedes el presupuesto a cero algunos de los fines

de la fundación opengela solo se pueden lograr con información que tiene la administración los estatutos de la fundación dicen que van y cito de manera textual otra vez

y subvenciones especialmente en supuestos de exclusión social vulnerabilidad social pobreza energética y colectivos de parados de larga duración pero cómo va a saber la fundación con carácter privado quiénes son parados de larga duración o quién es usuario vulnerable

todos estos colectivos que por supuesto tienen que ser asesorados lo tienen que ser a través de la administración quien es quien sabe

y la administración no puede ceder esa información de ciudadanos vulnerables ni de ningún otro a ninguna fundación proponen los estatutos están diciendo que desde servicios sociales quieren ceder datos personales a una fundación de carácter privado ustedes saben que esto no se puede hacer y si no lo saben la situación es peor de lo que me imaginaba sin embargo la propuesta que

aquí tiene más en debate si la fundación ha de ser privada o pública pública o privada y me alegra que ha dicho el señor fernandez de betoño que ellos entienden en la colaboración público privada pero cuando se va a financiar esta acción pública que tiene que ser pública con fondos públicos

por lo tanto nos abstendremos sin embargo a la propuesta de bildu pero tenemos nuestras reticencias con respecto a esta fundación

justifikatzen dituzten arrazoiak eta baita ere fundazio horren bideragarritasuna todos y creo que todos los grupos coincidimos en la importancia de las políticas de rehabilitación en euskadi esa cifra de que el cuarenta y tres por ciento de los edificios en euskadi se han construidos antes de mil novecientos sesenta y uno es un buen indicador todos sabemos ese esfuerzo pero es un esfuerzo que hasta ahora ha sido insuficiente ese esfuerzo

como en los planes del gobierno del estado por cierto ayer aprobados por la comisión

a los programas de rehabilitación en euskadi una noticia la de ayer que es una de las mejores noticias que hemos recibido en los últimos años

eso sí gestionar esos fondos con transparencia y con fidelidad a los objetivos que es la recuperación económica de europa y esos fondos además ahora hay que pelearlos para que lleguen

en sus justas proporciones a todas las comunidades autónomas y por supuesto también a euskadi y por eso es importante el debate también que tenemos hoy encima de la mesa

de movilidad transportes y agenda hace unos meses dijo que en esos fondos en esa partida de cinco mil ochocientos millónes de euros

que no solo informasen sino que hiciesen todo el ciclo completo con los agentes del sector a modo de ventanillas únicas

única en los barrios para atender a la ciudadanía para facilitar soluciones y en especial además un tema que nos parece importante y por eso igual que el señor fernández de betoño digo que no tenemos nada en contra de lo que es el proyecto en sí sino de cómo

que está enfocado como prioridad en los barrios vulnerables de euskadi

y además ese objetivo de rehabilitación desde nuestro grupo también lo hemos demostrado en los últimos años en todos y cada uno de los procesos de debate de los presupuestos con las partidas de aumento a las ayudas de rehabilitación lo que nos sorprende realmente nos sorprende es que el gobierno vasco señor arriola asuma un papel de actor secundario en esta película y ponga

privada de la empresa repsol el sesenta por ciento del liderazgo de las políticas de rehabilitación que se van a gestionar a través de opengela eso es lo que vemos en el preacuerdo la gestión y ejecución de la regeneración integral en euskadi en la comunidad autónoma del país vasco de una fundación privada en la que el gobierno vasco por mucho que diga no tiene la voz cantante dos de cinco mayoría repsol qué pinta qué pinta la fundación de repsol en este proceso por qué elevan a categoría de mantra en la respuesta que dio también en una interpelación en este parlamento

colaboren con lo público en la gestión de algunos asuntos pero esto

y leo textualmente la planificación organización gestión y ejecución de la regeneración urbana en euskadi en una fundación de una

religiosa no tendrá nada que ver con la lucha que hay entre las grandes multinacionales por los fondos europeos no hay otras formas de gestionar estas cosas nos sorprende señor arriola nos sorprende que se cree

aun más que sea de participación privada mayoritaria tres de dos para repsol

en la que se crea una empresa mixta una empresa público privada con un capital del cincuenta y uno por ciento público en la que nos garanticemos el control y la última palabra

si fuera una fundación por qué no una empresa totalmente pública

solo una empresa financiera no lo entendemos

por el gobierno vasco pero es que nos lo ponen a huevo la fundación repsol en manos de la política de rehabilitación en euskadi una opengela

como objetivos la mejora de la cohesión social la descarbonización y el cumplimiento de los acuerdos internacionales como el de parís el acuerdo del convenio marco de naciones unidas sobre cambio climático en el que se establecen las medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero

repsol alucino una multinacional

petroquímica que es la tercera emisora del estado español de ce o dos

de avance en las políticas de descarbonización decía al principio

aquí y en todas las instituciones en las que estamos las políticas de rehabilitación

son políticas de primera y son políticas que defendemos desde el primer momento

convencidos y lo llevamos haciendo muchos años que son políticas necesarias para

empleo para mejorar la calidad de vida de las personas y también para luchar contra el cambio climático pero se pueden hacer las cosas de otra

toda la ayuda del mundo para rehabilitar sus municipios eso es ayuntamientos y lo que debería hacer el gobierno vasco es liderar ese proceso y no dejarlo en manos de otros y además nos preocupa opengela por qué la fundación repsol y no una fundación diferente por qué esa empresa financiera y no otras empresas financieras

en qué reunión se ha decidido en qué criterios se basan para elegir una y no otra

esperemos también más de mil que se van a gestionar en euskadi

transparencia somos conscientes y no vamos a negarlo del reto burocrático que supone gestionar los fondos europeos y otras

y todo lo que ello conlleva pero volvemos a decir

la única administración el único sistema que soporta los vaivenes de las crisis económicas los vaivenes de gestionar la recuperación económica es el liderazgo de la administración pública por eso

creemos que es el momento de bajar la pelota pararse a pensar pararse a reflexionar si este es el mejor método para gestionar estos fondos europeos

llegar a los que tenemos que llegar que es a beneficiar a la ciudadanía vasca y especialmente a la ciudadanía vulnerable de euskadi y mejorar su calidad de vida y además luchar contra el cambio climático pensamos que hay tiempo de rectificar de gestionar desde lo público con la colaboración privada que haga falta pero en condiciones de igualdad

y asegurar que las condiciones de la rehabilitación en euskadi se hacen de esa forma y no para el lucro de unos pocos eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi hoy debatimos sobre la proposición no de ley relativa a la fundación opengela y en primer lugar debo resaltar

a decir que del resto de grupos de esta cámara y el gobierno sobre la necesidad de desarrollar un programa de intervención en los barrios con especial atención a los más vulnerables que pueda servir de modelo para su extensión a toda euskadi y con él lograr la mejora de las condiciones de vida de toda la población

y el avance hacia el objetivo de la descarbonización de todo el parque edificado en el año dos mil cincuenta en definitiva que nadie ni ningún lugar se quede atrás y antes de hablar del programa opengela voy a referirme al contexto en el que nace este proyecto

transición energética ecológica y la mejora de la cohesión social o la reducción de la segregación urbana y residencial en euskadi

que en el ámbito de las obligaciones referidas a los edificios y las viviendas se exige la calificación energética de todos los edificios existentes y que los nuevos o que sean objeto de reformas importantes sean de consumo energético casi nulo cabe recordar que el consumo energético de los edificios supone en torno al veinte por ciento del consumo total

lo convierten en uno de los sectores con mayor capacidad de mejora y aportación a la reducción de consumos energéticos y emisiones de gas de efecto invernadero

de betoño y también lo ha dicho usted que la dimensión del reto al que nos enfrentamos es realmente colosal en euskadi existen ciento ochenta y uno mil ochocientos sesenta y cinco edificios que albergan un millón ciento veintitrés mil doscientos ochenta y nueve viviendas escasamente el uno por ciento se pueden considerar de consumo energético casi nulo lo que significa que de aquí al año dos mil cincuenta se deberá intervenir en todos ellos si compartimos el análisis de los expertos que señalan que en el horizonte dos mil cincuenta el ochenta por ciento del parque edificado estará compuesto por edificios

coincidiremos también en que es necesario priorizar las actuaciones sobre la edificación existente

no es suficiente con disponer de un marco regulatorio adecuado son necesarias también medidas específicas de impulso estas medidas deben contemplar los incentivos adecuados el acompañamiento a los agentes y las movilizaciones de inversiones para avanzar hacia la neutralidad climática en el sector de la edificación a partir del año dos mil treinta

se requiere de la colaboración entre las administraciones públicas y las entidades privadas y la incorporación de tecnologías y cambios en un sector que se va a convertir en esencial en las próximas décadas como es el de la intervención en nuestras ciudades y entornos habitados no podemos obviar que a pesar del esfuerzo de las administraciones públicas y de las importantes inversiones realizadas durante casi cuarenta años año mil novecientos ochenta y tres para mejorar las condiciones de barrios y ciudades vascos

de vulnerabilidad muy alta o alta manteniéndose en esta situación las zonas declaradas como áreas de rehabilitación integral o áreas degradadas esto significa que las medidas y fórmulas de gestión y financiación utilizadas hasta el momento no han sido suficientes

las iniciativas de los ciudadanos chocan con grandes dificultades a la hora de conseguir la financiación necesaria

de rehabilitación en la actualidad los particulares que se plantean realizar estas obras o bien no pueden acceder a los prestamos pudiendo acceder al crédito en las condiciones que se les ofrecen hace que sean reticentes a recurrir al crédito para emprender estas obras y es aquí donde nace

desarrollado por un consorcio formado por entidades de carácter público y privado que tiene por objetivo desarrollar un modelo de intervención en los barrios de nuestras ciudades y pueblos posibilite su conversión en barrios energéticamente positivos climáticamente neutros que sean sumideros de carbono socialmente cohesionados amigables accesibles con integración de infraestructuras verdes y azules que permitan recuperar el espacio urbano para las personas

con este programa se pretende dar una respuesta a las necesidades de acompañamiento y gestión que este reto requiere con una red de oficinas de proximidad dotadas de personal formado y con la garantía de disponer de un instrumento de financiación que posibilite que todas las unidades convivenciales puedan acceder a una adecuada a sus condiciones y esto señor fernandez de betoño no se puede conseguir con los recursos públicos exclusivamente y como acertadamente apunta tampoco se puede dejar en manos del sector privado pero también es una realidad que para atraer el compromiso y los recursos privados es necesario que además esa colaboración público privada se realice mediante un sistema ágil

en coherencia con este planteamiento se pretende que el programa opengela extendido a toda la comunidad autónoma vasca tenga una gestión única y con coherencia en toda euskadi

de una entidad gestora que sea la que siguiendo las directrices y políticas del gobierno

como una política de interés general esta particularidad lleva a la conclusión de que la entidad gestora debe configurarse como una entidad sin ánimo de lucro

gestora del programa opengela como una fundación que pueda operar en todo el territorio de euskadi y sin ánimo de lucro que pueda establecer sistemas de colaboración con la administración pública

directamente suscrito por las personas y familias beneficiarias la administración puede participar como garante del programa pero en ningún caso se puede

la combinación de fuentes de financiación públicas y privadas planteada está de acuerdo con el enfoque promovido por la comisión europea y el banco europeo de inversiones que permita maximizar el impacto generado por los fondos públicos a la vez que proporciona un mecanismo

en conclusión la implantación del programa opengela facilita a los particulares el acceso a la financiación para realizar este tipo de inversiones en condiciones más favorables

que corresponde a los poderes públicos y esto además sin aumentar el gasto público ni la deuda los recursos públicos disponibles para

limitados y tienden a disminuir por la demanda concurrente de otras áreas del sector público

transporte público bienestar social etcétera etcétera y por eso una asociación con el sector privado puede atraer modelos de financiación innovadores capital privado y fomentar el apoyo

de edificios de hecho los recursos públicos correctamente estructurados sirven como base para apoyar programas de rehabilitación de edificios financiados con capital privado dispuesto a prestar

asequibles hay que reducir la percepción del riesgo en la actividad de financiación por eso se plantea la combinación del capital público con capital privado para la creación de un instrumento de financiación que permitirá cubrir la financiación hasta el cien por ciento de la inversión en los casos más desfavorecidos

para los que puedan acceder a la financiación opengela con este modelo los recursos públicos pueden ayudar a disminuir el coste y el riesgo de soportar financieramente el desarrollo del programa de rehabilitación de edificios en este momento

es de cinco esto garantiza una aportación de recursos privados para la financiación en modo de prestamo concedido a través de los recursos privados o en otros términos con la aportación de cada euro público se pondrán en funcionamiento cuatro euros de origen privado

izango dugu retos que yo diría que desde las instituciones públicas

también con entidades privadas basado en una visión compartida de futuro porque el país lo tenemos que construir entre todos y las acciones

trae hoy un debate de una proposición no de ley para paralizar la fundación opengela de la cual conocemos por lo menos hasta el momento que existe un preacuerdo para su creación las fundaciones son organizaciones aquí se ha hablado poco sin ánimo de lucro

a la consecución o a la realización de fines de interés general

por los estatutos y también por la ley guk uste dugu erakunde eta pribatuen arteko elkarlana gauzatzeko fundazioa formula

o participar en su constitución exclusivamente para promover la participación de particulares o entidades públicas o privadas en actividades de interés general

autorizada por el órgano competente en cada institución previa tramitación de un procedimiento

razones o motivos por los que se considera que mediante esa fundación se alcanzarán los fines de interés general legebiltzar honetan

preacuerdo para la creación de la fundación hori besterik ez daukagu bakarrik

bertatik a ver nosotros

por administraciones públicas existen ejemplos de fundaciones o sociedades que generan bienestar a la sociedad y que su acción es reseñable el caso de la opengela fundazioa es diferente porque

que da es que el gobierno vasco busca sustituir la iniciativa pública por la iniciativa privada con fondos

todos estamos de acuerdo en el fin del proyecto del programa opengela sin embargo lo que no estamos de acuerdo es que se salte el control de la concurrencia pública es decir solo son unas empresas a dedo las que van a decidir y esto se salta todo lo que hasta ahora del control público de la concurrencia como se ha dicho

energética de las zonas deprimidas pero hay que saber hacerlo bien y para eso tenemos los mecanismos públicos para hacerlo

a lo que tiene que ser este tipo de regeneraciones urbanas eskerrik asko larrea andrea elkarrekin podemos ezker anitza

helburuekin pero no hemos escuchado ni una sola razón

en el segundo turno nos sorprenden pero ni una defensa

repsol no hemos escuchado justificaciones basadas en datos

ninguna justificación y yo creo que es lo que buscaba la iniciativa

del dinero público todos estamos de acuerdo con esos objetivos de rehabilitación social y verde de ventanilla única de facilitar el trabajo a la ciudadanía de facilitar el trabajo a los gremios

de energía y con empresas de rehabilitación en euskadi y se crea un gran partenariado con empresas pequeñas medianas y grandes de euskadi por qué solo la fundación

el lehendakari estuvo hace un par de días con el presidente de iberdrola se podría

no hay nadie que nos haya explicado el motivo de firmar y de crear esta nueva fundación solo y exclusivamente con la fundación por tanto pues bueno es verdad que siempre miramos con detalle la participación privada en la parte pública aunque vuelvo a decir es especialmente importante pero que se haga en condiciones de competencia que se haga en condiciones de transparencia para que esos fondos luego se vayan a gestionar de forma correcta porque de nada nos sirve una ventanilla única

todo lo va a decidir la parte mayoritaria de esa fundación y vuelvo a decir por qué una empresa financiera en concreto y no kutxabank

o por qué no triodos bank que es un banco ético experto además en construcción sostenible digo yo no estoy haciendo de parte

ninguna alternativa concreta que tenga que plasmar el gobierno pero bueno opciones en el mercado hay y por qué solo

y no fundaciones con la obra social por ejemplo con la fundación de la bbk la fundación de la vital o la fundación kutxa

que se cree esta fundación en las características que está creada en estos momentos por mucho que los objetivos finales de opengela estemos de acuerdo

las cosas se tienen que hacer de otra manera eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

de la proposición no de ley presentada en cuanto a su punto primero y segundo y a la necesidad de no parar el proceso de constitución de la entidad

del programa opengela cuya denominación será opengela fundazioa en caso de culminar el proceso constitutivo

que exige de forma inmediata la articulación de instrumentos de gestión

al que se enfrenta el departamento de planificación territorial para lograr la

y esto hace imprescindible fomentar y desarrollar los mecanismos de colaboración público público y público privado necesarios para que se convierta en algo asumible

el departamento también es consciente de la limitación de los recursos públicos y la imposibilidad de asumir mediante líneas y programas de subvención

que requiere la actualización del parque edificado es imprescindible incorporar recursos privados que posibiliten financiar esas intervenciones el programa opengela como se ha señalado

obstáculos que frenan la realización de obras en inmuebles para mejorar su eficiencia energética y su la falta de acompañamiento y asesoramiento técnico la falta de acceso a productos financieros más adecuados y la ausencia de programas específicos para la población más vulnerable respecto al punto tres y cuatro de la proposición no de ley decir que en esta nueva

público privada administración por cierto muy competente señora larrea la administración puede jugar además un destacado papel en el momento de comprobar la viabilidad de los programas y de los proveedores de los servicios implicados en las intervenciones

que tienen que tener la capacidad suficiente y son dentro de lo posible locales valorar las medidas de responsabilidad social corporativa adoptadas por los potenciales proveedores retribuciones justas

contratación de personas con discapacidad igualdad de género conciliación etcétera supervisar que los programas responden realmente a los intereses públicos generales y locales

descritas y asegurar que los particulares reciben información clara y entendible y asesoramiento especializado que les permita conocer las alternativas las ventajas los costes y los riesgos

y en ningún caso habrá cesión de datos los datos personales desde luego los darán directamente los particulares

en definitiva hablamos de velar y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas en materia de rehabilitación de edificios y regeneración urbana integral cumpliéndose

es evidente que si la pretensión que lo es es lograr el éxito se debe posibilitar que todas las personas puedan acceder a una financiación justa y asequible hay que recordar que existen ya cuatro barrios que conforman el proyecto inicial txonta otxarkoaga aramotz y basaundi bailara a los que en breve se sumará el barrio andonaegi de

meatzaldea en el contexto de los planes de zonas de actuación preferente y la previsión de recursos importantes que pueden llegar de los fondos next generation para el desarrollo del proyecto de regeneración urbana integral incluida en el programa euskadi next dos mil veintiuno dos mil veintiséis todo lo señalado

la necesidad de creación de una fundación que por supuesto contará en su tramitación con los informes jurídicos y económicos necesarios colaboración

actor tantas veces mencionada y reivindicada y tan pocas veces visualizada para llevar a cabo las intervenciones de rehabilitación de edificios

vivienda y transportes y mire señora martínez hay un refrán que dice

y denota la facilidad con la que pensamos o sospechamos que otros

y es que de chiringuitos sabe mucho el líder de su partido así que por favor no venga aquí a dar lecciones

gracias presidenta buenos días consejeros señorías bien es un buen momento en este día de en estos días de amenazas para el campo

cuestiones que tienen que ver con los fondos con la negociación de la pac pues es un buen momento para hablar también de agricultura

de las necesidades del campo de la cadena alimentaria de un sector que es básico para nuestra subsistencia para nuestra economía

pandemia y que debe de seguir haciéndolo la política agraria con sus dimensiones

con los gobiernos autonómicos o el gobierno central las diputaciones forales en nuestro caso las organizaciones profesionales las

y todas las necesidades que hay que seguir implicando a europa en relación con estas cuestiones institucionales y políticas

en algunas cuestiones básicas y muchas de ellas

políticas medioambientales políticas económicas alimentarias pero también

en lo económico que es las subvenciones las ayudas el estímulo a esas labores que estábamos comentando tan básicas y tan esenciales

día catorce de mayo planteamos una interpelación constructiva a la señora consejera una interpelación que

vasco porque estamos en un momento muy

en relación con las negociaciones del plan estratégico español de la futura pac

la pac dos mil veinte pero que tiene que materializarse después

con clamorosas faltas de acuerdo en relación con el consejo la comisión el parlamento europeo pero también aquí

estrechamente y lo tiene que hacer desde luego el ministerio de agricultura con las comunidades autónomas algo que se echa en falta de alguna manera

declaraciones de las organizaciones de productores y

de comunidades autónomas echando de menos una mayor cercanía un mayor conocimiento sale desde luego en nuestra iniciativa y también en alguna de las reflexiones que hacen las enmiendas de totalidad que se nos presentan en relación con que hay que conocer más y hay que implicarse más en esa negociación españa

estamos integrados no puede y en esta negociación además no puede perder

no podemos perder no pueden perder los agricultores que es una sensación que en este momento

y se ha denunciado por parte de las organizaciones profesionales por parte de las organizaciones del sector que hay un riesgo de perder de perder recursos y de ir para atrás porque hay muchas cuestiones que se implementan pero no recursos

esa preocupación esa otra amenaza que pende sobre las políticas agrícolas las políticas ganaderas por las nuevas fórmulas planteadas

popular ciudadanos nosotros reivindicamos el carácter estratégico del sector agroalimentario vasco el sector agroalimentario español el sector agroalimentario español y su aportación a la economía más del once por ciento del producto interior bruto nacional y más de dos millónes y medio de puestos de trabajo generados

es un esfuerzo ahora que tenemos que hacer un planteamiento global además porque no va a estar sectorializado o por comunidades autónomas es un planteamiento contundente en relación con nuestras posibilidades y contra la necesidad de negociación su esfuerzo permitió

permitió mantener la actividad además en los tiempos más difíciles durante la crisis del dos mil ocho dos mil doce

contribuyendo así a crear riqueza en todo el país aquí también y en el ámbito rural a luchar contra la despoblación incluso a reforzar

en mercados internacionales como productos como un país como un estado atractivo por la calidad de los productos alimentarios la seguridad de los mismos y el alto valor de nuestra gastronomía también incluido ese tema pero

la modernización etcétera etcétera que se ha ido desarrollando también en tiempos de crisis este valor estratégico se ha hecho aun más visible con el papel fundamental que han desempeñado todos los eslabones de la cadena alimentaria para asegurar el suministro y la autonomía alimentaria durante la

ha funcionado bien todo ese sector todo el sector todo en su conjunto es decir

sin el compromiso de esa generosidad también de esa profesionalidad de agricultores ganaderos pescadores y en el papel central de la industria la distribución nos habríamos enfrentado a una crisis sanitaria y económica una crisis de abastecimiento de primera magnitud y eso no ha ocurrido quiero

que hay que preservar y hay que modernizar también y mejorar en esas claves donde la pac donde la política agraria común es el principal instrumento del que se ha dotado la unión europea para asegurar esa autonomía alimentaria y por eso

apostamos por su salvaguarda y porque cualquier cambio de modelo vaya acompañado de los necesarios estudios de impacto económico social y ambiental

que se introduzca para garantizar y conseguir una pac equilibrada ayude precisamente

de nuestro sector agroalimentario es algo que tiene que hacer en este caso

esencial que tiene que hacer y que tiene que hacerlo ya porque los plazos corren muy deprisa aún el gobierno de españa no nos dice que va a ser definitivamente el impacto que va a tener la pac no hay todavía datos el propio gobierno vasco

que han sido insuficientes que incluso planteamientos que se han hecho no los ve pero

y por eso yo creo que esos son los elementos que hay que valorar y por eso hicimos esa interpelación y hacemos esa moción para preocuparnos

para decir cuáles son los elementos que en este momento están sobre sobre la mesa

a los que hay que poner valor nosotros por eso presentamos la interpelación

veinte puntos que afectan a determinadas cuestiones para el futuro de nuestra agricultura hay más cultivos que

con determinados sectores más cultivos subvencionados hay más hectáreas

medioambientales y sin embargo no hay más recursos ese es el elemento fundamental de toda este momento político en relación con la futura pac que nos preocupa y que preocupa desde luego al sector de una manera

no se dan respuestas todavía en relación con qué pasa si hay muchas más exigencias si hay muchas más necesidades

esos recursos ese es el elemento fundamental y esa es la preocupación en el sector

ya se han posicionado desde luego con mucha claridad no hay más que leer

que nos mandan organizaciones profesionales vascas o del conjunto de españa

gran preocupación y a eso hay que responder nosotros hemos querido en nuestra iniciativa en nuestra moción instar al gobierno vasco a poner en valor

la relación que el departamento de la señora tapia tiene con el ministerio de agricultura pesca y alimentación

el marco del plan estratégico a poner en valor una serie de cuestiones que

relevantes e importantes y en ese sentido uno de los elementos fundamentales es el que he venido diciendo era comprometer los fondos específicos para la pac en el período dos mil veintiuno dos mil veintisiete por encima del período dos mil catorce y dos mil veinte y en su caso incrementarlos proporcionalmente si de la negociación se derivan nuevas exigencias de gasto y se van a derivar nuevas exigencias de gasto o sea que va a haber que incrementar desde luego

de la cofinanciación que deban aportar las comunidades autónomas eso es un elemento de carácter general está bien claro que nosotros tenemos nuestras especificidades

con lo que tiene que ser defender desde aquí comprometer más

y eso debe hacerlo eso lo tiene que defender desde luego el ministerio nosotros entendemos que también hay que aplicar

del futuro plan estratégico nacional es algo básico se echa de menos también

la enmienda del gobierno habla de anticipar información para que se pueda trabajar

que se vayan reuniendo y lógicamente ese es el elemento fundamental más rigor más conocimiento más información más transparencia

compatibilizar el acceso a otros fondos para permitir al sector acceder

del programa nacional de reconstrucción resiliencia dentro del next generation de la unión europea

previstos para cumplir con las exigencias de la promoción de la transformación digital de la competitividad de la transición ecológica facilitar la lucha contra el cambio climático

no nos cabe duda que el gobierno vasco también tendrá que es su planteamiento definir es un concepto de agricultor genuino vinculado a la producción

no solamente los partidos políticos sino el sector y los gobiernos los departamentos de agricultura de las distintas comunidades autónomas defienden un concepto de agricultor genuino

a la producción de alimentos con orientación de mercado apoyar a los pequeños agricultores productores y su papel en el mantenimiento de la actividad económica en el medio rural y la lucha contra la despoblación ese es el elemento fundamental y ahí está lógicamente el papel

claras del sector tiene que ser apoyado y tiene que ser fomentado facilitar desde luego con las medidas de la pac el acceso de los jóvenes a esa actividad agro ganadera y el avance de esa profesionalización de la que se está avanzando y precisamente es el elemento fundamental hacer atractivo el sector la incorporación al sector asegurar la estabilidad la innovación permanente también forma parte de esos otros objetivos no solamente los de la cadena alimentaria y la producción agrícola sino de la despoblación

faltar el cooperativismo es un elemento esencial dentro de lo que estamos hablando y dentro de las políticas que tienen que ser de apoyar el cooperativismo como uno de los

y fortaleza a las cooperativas y al sector impulsar la formación agraria y

profesionales el asesoramiento permanente desde las instituciones algo fundamental promover

alimentaria diseñando una reserva de crisis suficientemente dotada

de riesgos etcétera etcétera asegurar también el futuro de todos los agentes del sistema alimentario eso es algo que tiene que ser

a todos estos agentes básicos del sistema alimentario una seguridad en su trabajo

en el funcionamiento de los mercados no nos cabe ninguna duda promover con los mecanismos de la pac un mejor funcionamiento de la cadena de suministro alimentario como uno de los elementos también

en mayor medida impulsar una reforma inmediata de la digitalización

del medio rural que permita a agricultores efectivamente todo esto va a costar

cuesta y va a necesitar más recursos de los que en este momento no se dispone

impulsar esa digitalización no nos cabe ninguna duda que reconocer y valorar el papel que siempre han desempeñado

y prevención contra el cambio climático asegurando que el porcentaje vinculado a los denominados ecoesquemas esté siempre por debajo del veinte por ciento está bien claro que en este momento pues hay mucha preocupación

hay muchas más exigencias se han puesto muchos deberes pero no van acompañadas de los recursos necesarios por eso en ese sentido pues son

cuestiones y los planteamientos o las reflexiones que hemos hecho en nuestra moción ahí están y

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on guztioi bueno hoy nos toca hablar de la pac pero a mí me gustaría empezar hablando

sino porque creo que tiene que ver con la reflexión que traemos sobre el tema

en una explotación familiar al uso con vacas ovejas gallinas cerdos etcétera mis padres cultivaban la hierba los cereales y la remolacha que daban de comer a nuestros animales vendían la leche de oveja a la fábrica del municipio de al lado y goyo el lechero nos compraba la leche

en vitoria conocíamos al carnicero que vendía nuestros corderos y nuestros terneros porque nos los compraban directamente

pero en este escenario tan bucólico se trabajaba mucho y se ganaba poco para pelear de alguna manera esta situación empezaron a llegar algunas subvenciones y ahora sé que eran las pac

regreso a la agricultura y a la ganadería extensivas a la rotación de cultivos al barbecho a lo de antes

el modelo de explotación familiar de antaño es el que se quiere premiar ahora para recuperar la tan ansiada y necesaria sostenibilidad lo hemos dicho por activa y por pasiva se ha remarcado hoy también son estas explotaciones las que crean riqueza con su trabajo las que alimentan a la población con alimentos sanos las que conservan los métodos de producción tradicionales

la agricultura familiar sigue siendo clave en la presentación del medio ambiente de la biodiversidad del bienestar animal y en la lucha contra el cambio climático

por la liberación de los mercados por la desaparición de las cuotas de los derechos de producción solo entre dos mil trece y dos mil dieciséis se perdieron dos millónes de explotaciones familiares en la unión europea

para mejorar la imagen de los respectivos gobiernos sin un planteamiento coherente y serio porque la pac pretende rediseñar un primer sector que ella ha desfigurado y pervertido en los últimos cuarenta años arrastrando de nuevo al sector pero sin conseguir que este subsista por sí mismo es uno de los sectores en los que más

no los convierte en negocios solventes los que resisten es a fuerza de crecer para conseguir más derechos la tierra y los recursos del sector se concentran cada vez en menos manos de quienes reciben cada vez más subvenciones el veinte por ciento de los beneficiarios de la pac concentrando más del ochenta por ciento de todas las ayudas en la actualidad el cincuenta y dos por ciento de la tierra agrícola de la unión europea está controlada por solo el tres por ciento de los productores

controlan la mitad del mercado se uberiza el sector y así es imposible impulsar el kilómetro cero

ya no se cultiva ahora se fabrica no hay más que ver los macroinvernaderos que se van a instalar en tuesta una fábrica de tomates kilómetro cero

eta modu eraginkorrenean erabili ahal izango ditu queremos asumir nuestra responsabilidad y decidir de acuerdo con nuestras competencias qué tenemos que hacer

el desarrollo rural la sostenibilidad y un modelo de consumo justo queremos definir dentro del marco establecido en europa los instrumentos flexibles como la definición de persona agricultora

si queremos que las mujeres entren lo primero que tenemos que empezar es a cambiar el nombre persona agricultora genuina

queremos tomar medidas para promover la participación activa de la mujer el acceso de los jóvenes la investigación la digitalización la protección del medio ambiente

sí por supuesto pero mediante una subsidiaridad total de los dos pilares

es la manera de conseguir una pac más justa eficiente y simplificada que revierta en la consecución de un sector agrario vasco vivo cohesionado y con futuro

del sector primario que queremos para dentro de diez años porque de ello depende su futuro y debemos debatirlo desde aquí

alimentado con suero pensemos qué debemos hacer para que respire y se alimente solo para que sea autosuficiente la pac debe ser un mero instrumento

que sea lo que condicione qué cómo cuándo y hasta cuándo comeremos eskerrik asko

presidenta señorías la nueva política

dos mil veintitrés ciertamente es una de las tareas políticas del gobierno de españa con los gobiernos de las comunidades autónomas

y también con las autoridades de la propia unión europea así expresado esto ya manifiesta una enorme complejidad por lo tanto

es cada vez más cercano a esta fecha todavía no está el trabajo a su vez sobre el plan estratégico de españa continúa la pac nueva entra en vigor el uno de enero del dos mil veintitrés y terminará en dos mil veintisiete

ya que es condición necesaria para que la aplicación de la pac

la oportunidad para el acuerdo en europa volverá el día veintiocho y veintinueve de este mes en luxemburgo en la actualidad se puede considerar que después de tres años

estabilidad y seguridad a los agricultores y ganaderos que necesitan la pac el interés europeo es que la pac del futuro tenga una orientación

a tres objetivos el fomento de un sector agrícola inteligente resistente y diversificado que garantice la seguridad alimentaria la intensificación del cuidado del medio ambiente y la acción por el clima

y medioambientales de la unión europea el fortalecimiento del tejido socioeconómico de las zonas rurales

complementados con un objetivo transversal común en el bloque económico

de incrementar la competitividad y el poder de la cadena alimentaria en el bloque medioambiental

la protección del medio ambiente así como conservar el paisaje y la biodiversidad en el bloque rural y social se quiere apoyar el relevo generacional afianzar zonas rurales vivas y fortalecer la calidad de los alimentos y de la salud

y el medio rural en su conjunto vinculadas a cada uno de sus objetivos se elabora coordinadamente con las comunidades autónomas y teniendo como principales interlocutores a organizaciones profesionales agrarias

ambientalistas se trabaja también con el ministerio de transición ecológica y la comisión europea

las organizaciones y personas pueden participar el plan inicia su trabajo a partir de la propuesta de reforma de la pac realizada por la comisión europea mediante un grupo de trabajo de alto nivel que coordinar los trabajos de los subgrupos especializados

mientras se suceden las negociaciones entre ministros de la unión europea y se avanza en el plan estratégico en españa en estos días el ministerio de agricultura pesca y alimentación

anticipar el pago a partir del dieciséis de octubre de hasta el setenta por ciento de las ayudas directas de la pac y de hasta el ochenta y cinco por ciento de las de desarrollo rural esta medida podría permitir un adelanto de las ayudas directas

a los más de seiscientos setenta mil agricultores y ganaderos que las han solicitado en la campaña de dos mil veintiuno

en un año que ha seguido siendo complicado para todo el sector

actualmente ya se han iniciado los procedimientos para llevar a cabo los necesarios controles administrativos y sobre el terreno que permitan asegurar que las ayudas llegan a los agricultores y ganaderos que cumplen todas las condiciones para su percepción

que permitirá reducir los controles sobre el terreno que se organizan en cada régimen de ayuda que pasan de manera general del cinco por ciento al tres por ciento de los expedientes

de un contacto físico entre el agricultor y el controlador para respetar las recomendaciones sanitarias con estas medidas se conseguirá que no exista un retraso en los controles

que todos los años con todas estas medidas relacionadas con la solicitud única los controles de dichas solicitudes y el pago de los anticipos el gobierno busca que todos los agricultores y ganaderos de españa puedan recibir sus ayudas de la pac dos mil veintiuno sin problemas

también se trabaja intensamente en una de las principales novedades de la nueva pac que son los ecoesquemas se trata de un catálogo de prácticas voluntarias encaminadas a incrementar la sostenibilidad de las explotaciones en aspectos tan importantes como la protección de los suelos

la preservación de la biodiversidad o la reducción de emisiones en base al acuerdo del consejo de ministros de la unión europea de octubre

los estados miembros deben destinar al menos el veinte por ciento de los pagos directos a esta finalidad a este último respecto es necesario tener en cuenta que las negociaciones trilaterales entre el consejo la comisión y el parlamento europeo

señorías compartimos el interés político por participar en el debate sobre el futuro de la pac y por eso consideramos acertada la iniciativa del señor barrio sí tenemos alguna diferencia más sobre cómo

nos presenta una batería de compromisos a los que desde aquí no podemos responder porque algunos de los resultados que

dependerán de las negociaciones y acuerdos entre las partes y no de un posicionamiento rígido y casi cerrado como él propone de ahí nuestra enmienda de totalidad con orientaciones sobre los aspectos centrales que se están discutiendo en estos momentos en relación con el futuro de la pac y el plan estratégico que ha de permitir acceder a ella

asuntos como establecer regiones socioeconómicas sabiendo que las actuales

a la convergencia europea y además hay que reducirlas mucho

hablamos también de las características de los ecoesquemas que para poder recibir ayudas y determinados porcentajes son necesarios también que se vayan desarrollando

es un gran elemento de cambio hablamos de los resultados destinados a los pagos acoplados de la definición del agricultor genuino todos sabemos que la pac ha estado funcionando sobre inercias que ya no se correspondían con cierta

y se exige su ordenación desde la unión europea y por lo tanto

una gran oferta propuesta de cambio

de las relaciones de negociación entre el ministerio y las instituciones vascas en fin nosotros hemos tratado de posicionar una enmienda de totalidad que vaya

con algunos de los asuntos centrales de lo que tiene que ser la reforma de la pac porque es una nueva pac con exigencias además de la unión europea y en un contexto político y económico muy diferenciador porque no hay que olvidar que

hay una diferencia sustancial que es la salida de reino unido de la unión europea reino unido recuerdo que era un pagador neto a la hora de aportar recursos a la pac que en este momento ya no están y que por eso

fue apuntando a la posibilidad de que lo que no era posible financiar desde la unión europea a ya los estados miembros con sus compromisos

estamos ante unas nuevas circunstancias y estamos

estamos ante unas exigencias de actuación y de control mucho más importantes y mucho más dirigidas a la eficacia de estas ayudas a los que realmente están comprometidos y producen dentro del sector del y

digamos que se fija centra nuestros compromisos en esos aspectos más importantes bien

para el funcionamiento de la cámara al margen del asunto diría que

porque algún parlamentario se va a quedar pegado y se va a necesitar

efectivamente rioja alavesa está sufriendo de forma importante

recibimos ochenta litros de agua en apenas una hora en mi propia huerta también

son las explotaciones de los agricultores y ganaderos y también con piedra en relación

en principio que viene de como usted ha dicho de una interpelación a la consejera de desarrollo económico sostenibilidad y medio ambiente en el pleno del pasado catorce de mayo yo

que le podría apoyar pero creo que de alguna manera

y que no es otro de cómo va a quedar o cómo pretendemos que

comunitaria que se implantará a partir de dos mil veintitrés y por tanto me voy a centrar en la intervención en esta materia antes me gustaría hacer una pequeña historia de la política agraria común la política agraria común se crea en mil novecientos sesenta y dos por los seis estados miembros que componían en aquel momento la unión europea

fue durante muchos años la única política agraria que tenía la unión europea y es más llegó hasta a destinar el ochenta por ciento del presupuesto comunitario el fundamento en aquel momento de la política comunitaria no era otro que conseguir el autoabastecimiento de los países miembros ya que en aquel momento no se producía más del setenta por ciento de los alimentos necesarios para alimentar a la población veníamos de una segunda guerra mundial que había dejado muy diezmada a la población y por tanto también era un elemento importante

junto con la innovación la investigación agroalimentaria y en cambio también de los hábitos alimentarios

paso de ciento treinta una producción que sobrepasaba el ciento treinta por ciento de las necesidades alimentarias ya en la década de los ochenta el gasto agrícola se había disparado como consecuencia del coste

la aplicación de medidas de intervención y las ayudas a la exportación para dar salida

hicieron que las medidas fueran muy costosas para mantener la pac

y generaban muchas pérdidas a los países productores más pobres y que producían alimentos agrícolas preferentemente y por eso

comunitaria hay que recordar que en mil novecientos ochenta y seis el estado español se incorporó a la unión europea y además en el caso agrícola

es decir llegamos a la reforma prácticamente sin haber conocido

fue la primera gran reforma de la pac pudiéndose destacar como principales cambios el inicio de la transición entre la producción y las ayudas

y el establecimiento de medidas para la mejora de estructuras agrarias en aquel momento en el mil novecientos noventa y dos en negociaron unas condiciones para nuestra agricultura

euskadi que todavía hoy día nos permite beneficiarnos

la pac tuvo una nueva modificación en mil novecientos noventa y nueve que ya

y de nuevo en dos mil tres hubo otra nueva modificación donde se incorporó el pago único

que pretendía lograr una mejor orientación de las ayudas a los agricultores activos creo que no lo ha conseguido junto con un papel más preponderante de los aspectos medioambientales lo que se denomina

sostenible y medioambiental también con esta

a los sectores más vulnerables cofinanciando las medidas por los estados miembros

pudimos incorporar ayudas al sector de la remolacha del que se ha hablado hace un momento también vacas nodrizas vacuno de leche ovino

esas ayudas están vigentes actualmente y también se incorporó lo que se denomina primer pilar y segundo pilar de ayudas feader

de nuevo realizar cambios en el modelo de ayudas siguiendo un poco en la misma línea que en las últimas que yo

menos ayudas con más obligaciones y condiciones hoy día la unión europea destina el treinta por ciento de su presupuesto a la pac he dicho anteriormente que llegó a destinar el ochenta por ciento son cantidades presupuestarias importantes

al dos mil veintisiete y en la próxima reforma de la pac cuarenta y siete mil millónes al estado español pero

reduciendo progresivamente a lo largo de las diferentes reformas de hecho este año ya se han reducido el uno coma noventa y siete

lo que afectará a las explotaciones más vulnerables también está prevista una reducción en el año dos mil veintidós con lo cual

habrá menos ayudas a no ser que para algunas explotaciones las orientemos de forma diferente

hoy día ya debíamos conocer decía el señor barrio el diseño final de la pac bi mila hogeita hiru bi mila hogeita zazpi ya la unión europea tenía que haber terminado toda su negociación pero ya hemos sabido también que no ha habido acuerdo el parlamento vasco rechazó la propuesta de la comisión y por tanto no se ha podido aprobar el plan estratégico que además solo va a ser posible

único en cada estado la política verde que se quiere implantar y los denominados

son el caballo de batalla parece ser para llegar a un acuerdo es cierto también como dijo la consejera en la comparecencia del catorce o la interpelación del catorce de mayo que está habiendo reuniones con el ministerio y las comunidades autónomas desde hace meses y también

también se están sucediendo ya sabemos que va a haber un plan estratégico tanto para el primer pilar como para el segundo pilar con cada uno de los estados

continúa con su modelo de centralitis que tan de moda está en los últimos tiempos también aunque

de las comunidades autónomas para el sector agroalimentario vasco es trascendental lo que finalmente se alcance en la negociación

entrando en las propias medidas actualmente hay cincuenta y dos zonas productivas en el estado

a dieciocho en este momento en euskadi hay nueve y parece que se pretende reducir a siete dos de secano dos de cultivos

en este sentido proponemos establecer regiones socioeconómicas comunes

siguiendo el ejemplo que se va a plantear por ejemplo en baleares que así lo está haciendo el ministerio

araba gipuzkoa y bizkaia pero respetando la bolsa de derechos disponibles

económica vinculada a estos derechos en segundo lugar la definición de agricultor genuino va a ser otro pilar importante

las explotaciones agrarias prioritarias cuyo titular de la explotación es profesional y paga la seguridad social agraria debe ser el más beneficiado de las ayudas apoyando en definitiva la agricultura familiar vasca

a empresas agrarias marqueses o condes que tienen grandes superficies y que se llevan una parte importante de dinero

eco esquemas dentro del modelo de agricultura verde que se quiere impulsar desde el parlamento europeo y que se pretende que pueda llegar al treinta por ciento de las ayudas a recibir entendemos que

de fácil gestión y seguimiento que permitan mantener la competitividad de las explotaciones vascas y que no superen el veinte por ciento de las ayudas a recibir por explotación

financiación propia dedica a los pagos acoplados entendemos que tiene que

para aquellos sectores más importantes en nuestra comunidad como remolacha leche y ovino también vacas y de alguna manera y oleaginosos

efectivo que es lo mismo que la limitación de ayudas por explotación a partir de un montante de ayuda de sesenta mil hectáreas por explotación y año

redistributivo orientado a las explotaciones de menor dimensión por último en cuanto al segundo pilar también muy importante permitir un diseño de las intervenciones de euskadi conforme a las necesidades estratégicas de nuestro sector agroalimentario y asignar a euskadi unos fondos feader para el período dos mil veintiuno dos mil veintisiete atendiendo a su nivel

durante el período vigente todo ello

posible a la defensa de las personas agricultoras y ganaderas de euskadi ante la nueva reforma eskerrik asko suso jauna

vasca desde vox siempre hemos estado al lado de agricultores y ganaderos de nuestro campo de nuestro mundo rural uno de los grandes valores de nuestra región y también del resto de españa y hoy no podía ser de otra manera vivimos

en el cinismo y la hipocresía del globalismo que por un lado nos pide fomentar y aumentar las ayudas a nuestro campo pero luego por culpa del ecologismo ingenuo

europa debe centrarse debe entender que con la competencia desleal y con la mal entendida política verde nuestro sector primario está condenado

preferencia comunitaria unidad de mercado y defensa de agricultores y consumidores si queremos que los pueblos vuelvan a brillar si queremos

no solo basta con buenas intenciones y subvenciones sino que debemos hacer rentable también la vida allí en ese sentido en la moción del señor barrio

una mención más concreta y específica para un sector clave en nuestra región y del que dependen muchas familias como es la ganadería extensiva

de la ganadería y agricultura podremos poner freno a ese fenómeno tan duro y negativo para nuestra tierra que es el éxodo rural en cualquier caso

aborda temas importantes y sobre los que no nos podemos situar en contra en vox creemos que ese es el camino el camino de la recuperación real de nuestra fuerza no hay un mundo rural y un mundo urbano esa es una separación porque los dos ambientes forman parte de un mismo territorio que es españa y el uno sin el otro jamás podrían funcionar por lo cual agricultores y ganaderos

y nosotros tenemos la obligación de ayudarles con todos los medios que tengamos a nuestro alcance eskerrik asko

buenos días señor barrio decirle que

nos parece que la preocupación en relación con el campo y la naturaleza y la conservación del medio ambiente

es acertada en cualquier caso sí decirle que nos parece también bastante hipócrita e hipócrita por qué básicamente porque viniendo de una formación política que no hace más que abogar por

el capitalismo más salvaje y que a su vez en ocasiones miembros de su partido niegan incluso la propia existencia del cambio climático ya le digo nos parece un tanto irónico

que nos propongan soluciones a problemas que ustedes han creado soluciones por supuesto de corte liberal ustedes que han abrazado

hasta sus últimas consecuencias las políticas salvajes de libre comercio quienes han firmado y siguen firmando

canadá sin condicionalidades sin ningún tipo de condicionalidad pretenden ahora aplicar

para mantener la rueda en movimiento defienden ustedes

que han fomentado una competencia desleal en precios con países con menores costes salariales y menores restricciones medioambientales

presionen a la baja los precios de los productos de nuestros agricultores y ganaderos que actualmente están viendo peligrar su economía su modo de vida y sus tierras y termina fomentando la despoblación de estos pueblos

que incluyen algún tipo de tasa o arancel a los productos de terceros países que no han internalizado los costes salariales o ambientales no en su lugar

causada por sus políticas equilibrándolas a costa de dar ayuda con dinero público

por las políticas liberales que ustedes aplican en relación con la bajada de impuestos y también con la desinversión en sectores públicos para a su vez

luego respecto a los costes para los agricultores relacionados con cumplir con las exigencias del pacto verde europeo o los ecoesquemas o las condicionalidades ambientales de la pac

por dar ayudas una vez más para cumplir con la ley es decir aquellos límites que se van a establecer para percibir las ayudas directas de la pac

suponga a los agricultores y ganaderos ustedes pretenden compensarlo o en su caso en el proceso de negociación limitar los porcentajes

en ningún caso lo que le mencionaba hace unos momentos en relación con los productos tirados de precio que se aplican en base

apoyan en su punto número doce

lo que habría que hacer es que se aplicara la legislación vigente y controlar que no se produzcan ventas a pérdidas ya que

se siguen realizando y por otro lado sí que nos alegra que en uno de los puntos el veinte haga precisamente mención a lo que le estaba comentando y es que vienen a decir entrecomillado que se debe de efectuar

de los productores de terceros países pero a su vez reconociendo las disfunciones que todo eso supone siguen ya digo

de condicionalidad creemos que los agricultores

genera los problemas y quién hace que su sector cada vez esté más afectado y más en peligro

como pueden ser los referidos a promover la participación de las mujeres y de los jóvenes en el sector apoyar el

incluso también lo que se ha mencionado en relación con acertar con la definición del agricultor genuino pero ya le digo que a grandes rasgos y por lo que supone de irónico y de

tipo y porque creemos que realmente el fondo de la cuestión y el problema

a europa y a los agricultores y ganaderos tiene una connotación mayor que la respuesta que se dé desde la pac sino que creemos que tiene que ver también con su posición en lo que respecta a los tratados

al gobierno sí que creemos que es una propuesta bastante más pragmática

de la pac y las ayudas en euskadi sí que es cierto que echamos de menos nuevamente lo que estaba explicando ahora mismo que es una reflexión respecto a la responsabilidad que se tiene

pero en cualquier caso sí que nos parece adecuado las referencias que se hacen a clarificar los procedimientos de los pagos directos e indirectos simplificar la gestión y control de los

dichos fondos a explotaciones de menor dimensión así como también creemos correcto instar

de la nueva reforma de la pac y se asignen fondos feder adecuados para ayudar al sector primario sobre dicha

en que creemos que la reflexión en relación con cómo afecta la política europea a este sector concreto de la agricultura

también tiene que tener una mirada ciertamente más amplia y en este caso que en lo que respecta al tratamiento que se hace

debiese de haberse planteado y que en cualquier caso la iniciativa que plantea el grupo proponente en la medida ya digo en que

esa política de tratados de libre comercio y compensar dicha realidad

la pac medioambientales estas compensarlas a su vez con otras ayudas creemos que no es una política

incidiendo en que desde lo público

general en este caso desde las administraciones y en ese sentido votaremos en contra de la iniciativa original y en su caso nos abstendremos en la enmienda planteada por los grupos

presidenta tiene razón el señor prieto esto se pega uno aquí se queda pegado

muchas gracias mire señor soto se ve

ha venido del congreso de podemos y ha venido potente

y hay que decir aquí los mantras las cuestiones no podía pasar

ultraliberales bueno en fin yo creo que

hay cuestiones que le gustan y que le parecen bien y que comparte no o sea que curiosamente es eso no yo creo que las cosas

la verdad que tengo el honor de pertenecer a un grupo político

que ha sido protagonista esencial en los grandes desarrollos económicos

en europa o sea también ha apoyado otras iniciativas que usted no comparte los tratados internacionales o tratados de libre comercio u otras cuestiones que también nos han desarrollado que usted lo ve de otra manera

y de seguir haciendo las cosas bien y eso eso no se puede

hacer usted la crítica a usted es fácil un poco demagógica un poco mitinera bien ultraliberales privatizadores

las políticas comerciales le sirve para todo ahora para la agricultura también la ganadería

igual es que igual usted como miembro del partido de la oposición igual lo que pasa es que le he pisado yo la iniciativa no y la he traído yo en vez de usted pues bueno pues igual eso también le ha fastidiado y me quiere igual meter

como grupo parlamentario que lo que hemos querido tratar de esta manera como ya le dije el otro día a la señora tapia

y de tratar de influir en lo que tiene que ser un proceso de negociación que está abierto del que conocemos poco pero donde las comunidades autónomas también tienen que ser esenciales no eso tenemos que y en eso nos queremos emplear mira la señora etxebarria también

que inciden en el apoyo en que hay que seguir apoyando al sector

históricas y de necesidad y algunas críticas algunas cuestiones pero bueno nosotros lo que pretendíamos con nuestra moción es precisamente eso apuntalar fortalecer a las instituciones a través de medidas concretas en relación con lo que tiene que ser el futuro del sector y desde luego pues criticar o ver o rechazar o poner de manifiesto

esa amenaza de menos recursos para más políticas no y eso es lo que queríamos poner sobre la mesa usted y su

poder tejer en una cuestión tan compleja como esta y con la complejidad de las cosas un acuerdo un intento de transacción es complicado bueno yo lo que quería más que nada era traer el debate y poner de manifiesto la necesidad de que

por esta política tan importante europea pero que nos afecta tan íntimamente y eso es lo que he tratado de hacer

votación separada de alguno de los si me lo permiten de algún punto de su enmienda de totalidad

imposible en este momento no la estrategia es la estrategia la que se nos ha mandado que sea la que tiene que ser la que

en este proceso negociador pero ha sido así los estados tienen que hacer su plan estratégico y a españa le toca el suyo lo que pasa y lo que nosotros queríamos es que españa haga el mejor plan estratégico

y que tengan elementos de juicio y que puedan incidir no y que puedan trasladar algunas de las cuestiones que nosotros hemos querido traer

es decir ante se refería también el señor suso a la falta de acuerdo en

o sea que hay un elemento y una complicación y además

profesional con los reglamentos que desarrollan los momentos los años veinte y veintiuno este momento de transición

es difícil ser más verde cuando los números cada vez son más rojos es decir eso lo decía un representante de una organización profesional y tiene razón hay más exigencias

de las políticas medioambientales está bien claro que se exigen para las que

y en este momento no los hay y esas son las cuestiones también un importante informe

de que ha sido muy importante la pac pero no ha sido suficiente para el desarrollo territorial de zonas rurales suficiente es decir que

más esfuerzos para hacer retos económicos medioambientales sociales a los que se enfrentan las zonas rurales y el empleo o sea nosotros lo que queríamos traer es eso de que en las comunidades autónomas se trabajen con fortaleza en relación con que se haga la mejor pac

eskerrik asko mahaiburu andrea me parece que del debate de hoy se desprende una gran preocupación sobre todo

por las crecientes exigencias y es comprensible me parece que es comprensible

en nuestra opinión lo que nos debe preocupar más que lo anterior es la manera de conseguir que en todo el sector primario

por encima de los costes de producción para todos los productos creo que eso nos haría un poquito menos dependientes de la pac para empezar entre otras cosas

único derivado de la negociación europea es una realidad pero bueno me gustaría puntualizar que hay maneras y maneras de hacer ese plan estratégico que está la subsidiaridad que se puede otorgar a las comunidades autónomas y que se trata de respetar realidades

plantea una cuestión que me parece que es muy de fondo y que sería bueno que le dedicáramos también algún tiempo pero con una cierta sinceridad en el debate

dice el señor barrio no queremos que pierda ningún agricultor queremos que como mínimo tengan la financiación anterior e incluso que la mejoren

nos expresamos en esos términos que hablemos de cómo es la administración institucional de cómo debe ser y es indispensable que hablemos de la política fiscal porque

una unión europea que tiene un miembro muy relevante menos que pagaba y pagaba mucho con el mismo presupuesto pueda conceder más ayudas

tenemos la vía de hacer más unión europea o menos

queremos dotar a la unión europea de más presupuestos para que el principal gasto político que es este tenga más recursos o queremos mantenerla en un escenario

desde el gobierno de españa o desde los gobiernos autonómicos para ayudar al sector muy bien y en ese caso estamos dispuestos a una cierta fiscalidad también a nivel de españa o a nivel de las comunidades autónomas para incrementar recursos porque claro su política es en el caso de la agricultura más recursos pero en el caso de la política fiscal menos impuestos sabe que es imposible se puede mantener en un discurso pero no se puede mantener en una realidad y por lo tanto un asunto absolutamente de fondo y además hay un elemento al que tampoco

cargarlo de expectativas falsas incluso expectativas demagógicas la nueva pac es una pac que quiere

y grandes compromisos y el compromiso verde es un compromiso verde

estratégico de futuro importantísimo para toda la unión europea

pero la realidad es que la nueva pac

y esto evidentemente recae sobre quién trabaja el campo no solo sobre quien trabaja de campo pero recae sobre quien trabaja el campo

a la que nos tenemos que enfrentar y por tanto eso va a comportar

y no va a generar satisfacciones al cien por ciento entre el sector por ejemplo la pac quiere definir y el plan estratégico

el agricultor y quién es el ganadero porque usted sabe que por la inercia por la inercia de los años yo diría de las décadas a través de la pac

y resulta que tiene ganado de cebo hay quién cobra porque es agricultor productivo

porque tiene acreditado un ganado que si vas a buscarlo ya no está claro todo esto hay que ordenarlo y esto es un mal

del gobierno actual o solo del gobierno actual también lo es pero no solo bueno pues tenemos exigencias políticas que se hacen desde europa que las tenemos que resolver hay quien tiene la pretensión de que pueda tener ayudas en función

porque debe ser que lo geográfico da un plus pertenecer a una región tiene necesariamente que dar un plus

se está planteando que lo que se agrupe sean productos homogéneos sean cultivos homogéneos sean

producciones homogéneas y no simplemente o fundamentalmente una cuestión de carácter geográfica claro todo eso ha venido para ser incorporado y cada vez más

esas exigencias que nos hacen mucho más modernos que nos hacen más eficaces más comprometidos con el medio ambiente

más sostenible y mejor pues también nos afectan a nosotros y tenemos que responder a eso y no vale simplemente con hacer la postura demagógica que no lo digo específicamente por nadie eh pero no vale con la postura a veces demagógica en los discursos de querer abrazarse el agricultor y el ganadero diciéndole aquí estoy yo

no se habla mucho se ha hablado en otros tiempos mucho más y por eso creo que traer debates de este tipo está bien yo creo que la moción que traía el partido popular que venía de una interpelación del catorce de mayo hablaba de la pac y por tanto

para hablar de la pac y he hecho algo de historia porque luego

efectivamente el modelo el marco puede que no nos guste pero en este momento es lo que tenemos

en bruselas y yo quiero que este parlamento si es posible traslade a aquellos que van a diseñar el plan estratégico del estado en colaboración con las comunidad autónomas

y efectivamente puede ser que el marco no es el que más me guste y el modelo tampoco pero como decían

y por tanto es lo que tenemos y sobre lo que tenemos que no vamos a cambiar es donde queremos o no vamos a cambiar sustancialmente si me permiten

y en ese sentido por tanto creo que las propuestas que hacemos son las que más importancia tienen

yo también echo en falta un modelo distinto de negociación de la pac un modelo distinto en el que se tenga en cuenta a la europa de las regiones ni la propia unión europea

dentro del estado no está la unión europea ha dicho que solo hay un plan estratégico y

no es el modelo que más me guste pero en ese sentido tengo que digamos colaborar en hacer de ese plan estratégico

dentro de las propuestas que hemos hecho también hay diferencias con las propuestas que hace el ministerio nosotros entendemos que el agricultor genuino es aquel que tiene que tener más de un cuarenta por ciento de ingresos procedentes de la actividad agraria y además tiene que ser agricultor profesional

tiene que pagar la seguridad social agraria no creo que se consiga este nivel de porcentaje

también creemos que los ecosistemas ecoesquemas perdón no tienen que ser

se compense por hacer algo sino que se incentive hacer eso es decir que desde

se lleven a cabo ese tipo de tareas porque realmente

su desarrollo y no se compensa porque si compensa estaríamos hablando no

pero hay un tema que me preocupa muchísimo también qué va a ocurrir con toda la superficie que actualmente

aunque está declarada de viñedo de pastos de frutas y hortalizas nosotros en euskadi no tenemos

cobramos por la que tenemos y no tenemos ninguna superficie más

en ese sentido este porcentaje puede suponer un catorce o un quince por ciento de todos los derechos globales del estado de todos

a las superficies de pago en ningún momento se incorporan actualmente

en lo que cobre cada agricultor por los derechos correspondientes y en ese sentido sí que me preocupa y me

la propia disminución y porque dentro de poco

de hectáreas existen de este tipo hectáreas que están declaradas pero que no cobran y esto es

a un debate electoral en una comunidad autónoma

que parte de esas hectáreas se incorporen a los pagos y por tanto reduzcamos el número de ingresos que reciban nuestros agricultores y ganaderos vascos

espero que sigamos manteniendo el modelo que ha venido realizándose hasta ahora en los anteriores planes de modificaciones de la pac no se incorporaron sobre todo en el último y espero que en los próximos meses tampoco se haga

el plan estratégico del estado y podamos seguir manteniendo el nivel de ayudas al sector agrario vasco eskerrik asko eskerrik asko

arazorik nola el cinco por un lado el siete por otro y los otros juntos

refleja los compromisos adquiridos por todos los países firmantes para garantizar el acceso de todas las mujeres y niñas a los servicios de salud sexual y reproductiva el derecho y el acceso a la educación sexual el reconocimiento y respeto